nos trae el señor barrio hoy un asunto muy interesante que nosotros

mejorar y concretar con una enmienda que finalmente hemos decidido retirar y plantear como asunto específico como continuación y apunte concreto

a aprobar en este pleno porque tengo que reconocer que la moción del señor barrio así como su interpelación de hace unas semanas marcaba un buen camino el de recuperar un buen hábito y avanzar en unas buenas bases alejadas de cualquier interés partidista por parte del proponente

en que realmente este era un paso de mejora respecto

y se refirió de esta manera prácticamente exclusivas del grupo nacionalista como si no hubiera habido otras aportaciones y participaciones en el intermedio hizo un paréntesis fantástico

saltándose efectivamente las iniciativas y aportaciones que hubo en el dos mil once que precisamente eran enfocadas exclusivamente a la sanidad y que significaron un gran paso como ha reconocido y declarado aquí

como digo tanto el planteamiento presentado hoy en la iniciativa y en el discurso de defensa de esta transacción

no hay ningún problema e incluso el señor consejero en la interpelación defendió sobre todo el código ético aprobado

en el que afirmaba que estaba en un buen momento y con gran rigor porque acababa de cesar precisamente al gerente de la comarca interior

un cese aplicado por la intervención o por la aplicación del buen gobierno del código ético que se sumaba

también por unas contrataciones por las que nos habíamos interesado los socialistas pero también al margen de contrataciones el cese del jefe de tráfico de la ertzaintza por una conducta que efectivamente no había sido muy ejemplar

todo esto venía siendo recogido por un medio periodístico

al grupo nacionalista vasco y en el que se afirmaba que al gobierno no le temblaría la mano como demostraban estos tres ceses por aplicación del código ético y nos alegramos por ello hemos vuelto a mirar en irekia el código ético al que se remite el consejero y bueno

son las referidas a evitar cualquier sospecha de favoritismo sobre todo a que las decisiones estén fundamentadas

ágiles y convenientemente razonadas el compromiso de remover los obstáculos que impiden la equidad naturalmente estamos totalmente de acuerdo con todo ello y como esta es la guía que invoca el consejero y como existe aunque no lo recordó el consejero como el consejo asesor del buen gobierno que específicamente se aplicó para la sanidad pediremos

la participación del consejo asesor de buen gobierno hoy no nos quedaremos solo en reconocer que esta fue una buena iniciativa que sirvió como precedente

pediremos por tanto que se siga avanzando en esa línea y que tengamos en cuenta también otras iniciativas y reflexiones compartidas en este mismo parlamento y en este parlamento en la pasada legislatura

sobre la forma de atajar irregularidades en las contrataciones me estoy refiriendo ahora a un avance muy concreto tanto del código ético como de la implicación del código asesor de buen gobierno para la sanidad porque

que ocurrieron y que mostraron una irregularidad

pendientes de resolverse en los juzgados también creemos que hay que fijarse más en lo que ya es un clásico en los informes del tribunal vasco de cuentas públicas donde se señala que el espacio para las irregularidades se ve favorecido porque hay pequeñas contrataciones que quedan al margen de los criterios de publicidad

de cuantía menor así que plantearemos que ese consejo asesor pueda emitir un criterio no décimos que tenga que impedir

gestión que se tenga que hacer mediante la contratación menor sino que se marque un criterio de

se marque un criterio que evite la irregularidad como saben

control de las contrataciones que realiza el gobierno en muchas ocasiones no se recibe la información solicitada

y razonadas que establece el código ético también aquí insistimos en que se mejore el cumplimiento del código ético porque son numerosas las ocasiones en las que los responsables de gobierno se remiten a la legalidad

para justificar contrataciones que simplemente y sin prejuicios queremos conocer desde la oposición hoy ha quedado el debate centrado

y del código ético que por supuesto vamos a votar a favor y dado el apoyo que tanto el consejero hace unas semanas como la enmienda de transacción que hoy se aprobará

en este camino suponemos que también se aprobará la iniciativa de este grupo parlamentario en ese sentido que vamos a proponer

próximamente en este sentido volver a ratificar nuestro apoyo a la transacción y sin nada más muchas gracias

zurea da hitza sí muchas gracias
presidenta desde el escaño con su permiso para agradecer en primer lugar a la señora roncal y al señor

y coincidir plenamente con la señora roncal este es un documento vivo y además sobre cuyas bases sobre las bases de este documento y de estas formas de entender la actuación en la asistencia sanitaria hay que seguir avanzando y desde luego los planteamientos que se pueden hacer

sobre la renovación de nuestra sanidad en las claves de acomodarlas a esos códigos

y en ese sentido agradecer su posición la señora ubera pues como siempre no la señora ubera tratando de descalificar la iniciativa porque claro a eh bildu lo que le gusta son los debates épicos van del big bang al apocalipsis

lo que es intermedio lo que es la búsqueda de la moderación lo que es la búsqueda de los planteamientos constructivos pues qué le parece pues no se concreta en nada son generalidades

antes de haber hechos tiene que haber palabras y desde luego hemos planteado que este código ético sobre el que fundamentamos esta iniciativa

está orientado a los profesionales es un código ético efectivamente claro es teoría

son compromisos de la administración yo le he hablado antes de una reflexión estratégica

alguno de los grupos de eh bildu entonces votaron a favor conjuntamente

con euskal ezkerra y se plantea ahora estamos renovando permanentemente

ese tipo de planteamientos éticos vuelvo a decir a eh bildu está bien claro que en esta legislatura solo

del apocalipsis que es el planteamiento permanentemente planteado si hay un debate centrado si hay un debate de reconocer buenos elementos de gestión de seguir aplicándolos de preocuparnos por ellos y de entender que esas son las claves de la gestión

generalidades bueno pero estamos acostumbrados desde luego a esa cuestión mire ayer tuvimos una sesión de la comisión de salud

triste y dura en la comisión de salud y sabemos que si no hubiese fundamentos éticos de estas características

saludamos que podamos seguir hablando de la ética teóricamente para luego aplicarla prácticamente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna norbaitek hitz egin nahi du

gaur arazo zehatz batekin hitz egitea nahi dugu hoy queremos centrarnos en el debate en la ejecución de las penas sí pero no en una generalidad

que por sufrir graves enfermedades son acreedores inmediatos del derecho a la libertad hablamos de presos que merecen urgentemente

únicamente por su deteriorado estado de salud sin otra consideración nos referimos a personas

grave e irreversible dolencias que la prisión no solo es incapaz de atenuar sino que obliga que hace empeorar una situación dificultada por su aislamiento del mundo externo por la falta de permeabilidad de una institución penitenciaria que dificulta su

acertado su seguimiento médico su terapia la reacción en caso de una emergencia una situación añadida además a la dispersión espacial

de su lugar de origen una situación de encarcelamiento que afecta a personas enfermas y a otras que sin estarlo tienen una situación homologable superan los setenta años y aún permanecen en prisión

por tres razones una primera por legalidad una segunda por humanidad y una tercera por suponer una clara demanda social referido a la legalidad expresar que la aplicación normalizada ordinaria de la ley conllevaría su inmediata puesta en libertad

han accedido a esta situación de libertad condicional o de prisión atenuada si bien ese camino posibilista realista

baina ez bestelakoak egun kolektibo horren bederatzi lagun daude etxean preso son casos que nos interpelan y además nos competen

a una institución pública cuales instituciones penitenciarias cierto es que no dependemos no disponemos de esa competencia pero precisamente al no disponer de ella debemos de velar con más ahínco porque quienes la tienen la apliquen acorde al a ley acorde al derecho acorde a ese derecho de las personas presas de acceder a la libertad condicional

recientemente una solicitud de ser traídos a cárceles de euskal herria y han solicitado ser puestos en libertad en atención su situación personal es ahora cuando se debe y se debe sustanciar por conduzco esa solicitud no hay disculpas para no hacerlo no hay disculpas para no aplicar la ley de manera ordinaria sin ningún tipo de restricción consideramos que imponer requisitos o condiciones a la puesta de libertad de personas enfermas

para satisfacer otras prioridades o intereses políticos

colocar un condicionante poniendo en el otro plato de la balanza la posibilidad o la imposibilidad de apurar lo más o menos que les quede de vida no puede ser considerado sino un tratamiento contrario

donde quiero apuntar ese segundo criterio de humanidad que mencionaba osasunerako eskubidea eskubide unibertsala da pertsona guztiek

alcaldes de municipios vascos a los que pertenecen varios presos enfermos nos expresaron su preocupación

que realizamos preocupados porque en vez de darse pasos adelante

tal vez en algunas circunstancias se realizan hacia atrás recientemente uno de los presos gravemente enfermos que se encontraba cumpliendo prisión atenuada en su domicilio

tras la confirmación de su condena por parte del tribunal supremo

recorrió el camino opuesto al que hoy queremos aquí marcar algo que nuevamente nos llama a la alarma de la involución

un trato sensible comprensivo con esa situación que atraviesan por fin la referencia a la solicitud ciudadana que es

los datos ofrecidos recientemente por el sociómetro

direla pentsatzen dugu esperemos que no tengamos que retrasar ni un minuto más el alejamiento y la liberación de los presos enfermos y de quienes superen los setenta años de edad porque es su derecho

porque es de humanidad y porque es además lo que la ciudadanía nos demanda besterik ez eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta eh bildu con esta iniciativa se refiere a los únicos presos que les interesa es decir a los presos de eta a los que están histórica

digo esto para aclarar desde el principio qué es de lo que estamos hablando y qué es lo que ha venido a defender aquí eh bildu han venido a defender a los presos

los puentes están tendidos son las leyes fin de la cita grande marlaska

están tendidos son las leyes afirmaban los presos de eta recientemente que podrían aceptar que su excarcelación se produjera utilizando cauces legales decían en concreto que podríamos aceptar que nuestro

pretenden la impunidad se efectuase utilizando cauces legales aún cuando ello

de nuestra condena creo que en este punto concreto

recordar la legalidad vigente y recordársela por cierto también al gobierno de españa para impedir que se produzca ningún tipo de impunidad

los presos de eta no están sometidos a ningún régimen penitenciario excepcional cumplen sus penas con arreglo al código penal y a la ley general penitenciaria

radicalmente falso que los responsables políticos estén quebrando los pilares básicos de los derechos humanos como dice la justificación de la iniciativa

que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión los requisitos para acceder a la libertad condicional son estar clasificado

haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social según establece el código penal

positivo cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas efectivamente si se niegan a colaborar con la justicia que es lo que está ocurriendo

es que no están reinsertados ni quieren reinsertarse y además no cumplen uno de los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley

con la única condición de volver al centro para dormir la decisión de los grados de cumplimiento recae sobre instituciones penitenciarias

señala que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales

además de los requisitos previstos por el código penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros establecidos en esa misma ley que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada organización

bien para atenuar los efectos de su delito bien para la identificación captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas para obtener pruebas o impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones

o con las que haya colaborado para que se considere que concurre una colaboración activa con las autoridades el condenado deberá cumplir los siguientes requisitos colaborar par impedir la producción de otros de delitos por parte de la banda armada o grupo terrorista colaborar para atenuar los efectos de su delito colaborar para la identificación captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas

para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado por tanto para acceder al tercer grado o a la libertad condicional nuestra legislación exige con las autoridades cosa que los presos de eta no han hecho siguen sin hacer y no tienen intención de hacer en el futuro por lo tanto la ley es clara y nuestro compromiso de impedir que haya como demasiados pretenden ningún gramo de impunidad también en relación al acercamiento en lugar del cumplimiento de penas es una facultad

de la administración el ministerio del interior es el órgano competente para decidir los traslados o acercamientos de reclusos la dispersión de los presos es una medida amparada

respaldada por el tribunal constitucional su objetivo es precisamente facilitar la resocialización

no quiere reinsertarse es una inmensa falacia sino que lo que básicamente quieren es salir cuanto antes de la cárcel es decir gozar

impunidad posible finalmente el artículo noventa y dos del código penal prevé la posibilidad de que reclusos mayores de setenta años o con enfermedades muy graves puedan optar

el artículo no opera de manera automática y en absoluto consagra

para concederla el artículo noventa y dos obliga al juez a ponderar la peligrosidad social del sujeto por lo tanto se marcan una serie

una serie de requisitos y en este caso concreto la decisión la toma la junta de tratamiento del centro penitenciario unos requisitos que deben cumplirse

y que los presos de eta no cumplen en absoluto en la actualidad por lo tanto para acceder a beneficios penitenciarios la ley señala de requisitos que deben cumplirse para aspirar al acercamiento la decisión discrecional corresponde a la administración para excarcelar a presos enfermos la decisión es de la junta de tratamiento del centro penitenciario y se establecen también una serie de requisitos que son meridianamente claros

a mayores de setenta años lo mismo una serie de requisitos que deben cumplirse en conclusión las iniciativas de eh bildu

defender la impunidad de los presos de eta nuestra enmienda lo que pretende y es algo que hemos defendido en este parlamento en varias ocasiones es

defender a las víctimas del terrorismo e impedir que existan ningún tipo de impunidad que es el propósito de eh bildu ese es el propósito que tiene eh bildu excarcelar cuanto antes a todos los presos saltarse la legalidad vigente saltarse los principios éticos más elementales y ante esa pretensión nosotros lo que décimos es que vamos a defender

a la sociedad decente y al cumplimiento de la ley y también cada uno de los requisitos establecidos en la ley de ahí nuestra enmienda para que este parlamento defienda la necesidad de resolver todos y cada uno de los crímenes cometidos por eta que a día de hoy siguen sin estar

para que este parlamento inste al gobierno vasco y al gobierno de españa a que se comprometan a llevar acabo todas las actuaciones que sean necesarias para promover

no resueltos de modo que podamos acabar con cualquier tipo de impunidad que socave la dignidad de las víctimas y de la sociedad por eso proponemos instar también

que aplique a los presos condenados por terrorismo condicione para el acceso a cualquier tipo de beneficio penitenciario cada uno de los requisitos establecidos en la ley que son meridianamente claros el requisito de colaborar con la justicia los presos de eta siguen sin querer colaborar con la justicia este gobierno y el gobierno de españa debería condicionar cualquier tipo de beneficio penitenciario de cada uno de los requisitos cosa que en los últimos tiempos y creo que históricamente no se ha hecho por lo tanto es un llamamiento que nosotros hacemos a este parlamento al gobierno vasco y también al gobierno de españa que garanticemos entre todos que no pueda haber ningún tipo de impunidad y como decía al principio

gracias señora presidenta la política penitenciaria que defendemos los socialistas es conocida la explicó de forma extensa

lo volvió a hacer en un pleno en febrero de dos mil doce

para que se vote en este pleno una posición que propicia que todos aquellos presos terroristas condenados por terrorismo que quieran reinsertarse

si cumplen todos los requisitos y que también aquellos presos enfermos que cumplen los requisitos sean excarcelados pero muchos de los problemas que estamos debatiendo y la solución a los problemas de los presos condenados por terrorismo están en manos de los presos

está también en manos de eta porque si eta se disolviera definitivamente

si los presos manifestaran con mucha claridad individualmente su alejamiento

aceptaran cumplir todos los requisitos de nuestro ordenamiento jurídico y de la legislación penitenciaria y reconocieran el daño injusto causado

y cuando hablamos de reconocimiento injusto del daño causado no estamos como algunos dirigentes de sortu dicen

a los presos de eta estamos simplemente pidiendo que se cumpla la legalidad en todo caso lo que nunca vamos a hacer es colaborar con ustedes en la desmemoria para que se olvide lo que ocurrió en este país ni mucho menos van a contar con nuestro apoyo para que los tratemos como héroes porque siempre recordaremos

y cometió actos terroristas en euskadi y que están condenados por eso y por último

no estamos en este pleno hablando de presos y presas vascas no están condenados por ser vascos o vascas

de los que estamos hablando son presos condenados por cometer actos terroristas asesinatos cometer muchos actos terroristas

tampoco aquí va a contar con nosotros para hacer una política de desmemoria siempre recordaremos lo que ha sido porque recordar lo que pasó es la mejor forma de construir el futuro

y permite por razones humanitarias y de dignidad personal el paso al tercer grado y la libertad condicional a los presos enfermos muy graves con padecimientos incurables

razones humanitarias y dignidad personal rasgos señor maneiro que también caracterizan a las sociedades decentes no es exigible en este caso por tanto más requisito

de esa situación y de eso es de lo que estamos tratando hoy de eso y de nada más no de otros debates tangenciales no de los periodos de eta en general y su futuro hablamos de presos enfermos graves

es clara y concisa primero fija como objetivo de trabajo de la ponencia paz y convivencia porque así

la política penitenciaria que debe ser tratada y consensuada en este parlamento para poder ser propuesta posteriormente al gobierno del estado segundo

a los presos con enfermedades graves e incurables y tercero insta al lehendakari a continuar con las acciones que viene desarrollando desde el inicio de su mandato

esta es nuestra postura y no otra esto es lo que sometemos a su consideración

volvemos a debatir una cuestión relacionada como decía el señor ares no con los presos vascos sino con los presos de eta y como siempre que eh bildu realiza una proposición sobre esta materia pretende instalarlos en la ceremonia de la confusión

son las señas de identidad de las iniciativas presentadas por eh bildu por lo tanto es necesario desterrar conceptos equivocados

desde la verdad y ante tanta manipulación por tanto lo que conviene es arrojar

sobre todo en materia legislativa tal y como os he dicho aquí el artículo tres de la ley orgánica general penitenciaria establece

siendo la administración penitenciaria la encargada de velar por la vida la integridad y la salud de los internos

se les facilita una atención sanitaria de carácter integral que incluye medidas tendentes a la prevención curación y rehabilitación de los internos equivalente a la dispensada al conjunto de la población

con recursos y profesionales sanitarios propios así como con acceso a la atención especializada a través del sistema nacional de salud por tanto nuestro sistema legal ofrece a los reclusos los medios adecuados para garantizar su derecho a una adecuada atención sanitaria bajo cualquier circunstancia también

para la excarcelación de los presos gravemente enfermos

según informe médico con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad para concretar los supuestos en los que se debe aplicar este precepto legal

instituciones penitenciarias dictó una instrucción la uno barra dos mil donde fijaba los criterios mediante los cuales se valora si una enfermedad debe ser considerara como muy grave y si existe un riesgo patente para la vida del recluso

los servicios médicos deben comunicar a instituciones penitenciarias para que según lo establecido en el artículo noventa y dos del código penal

que a la hora de resolverlo valorará otra vez como decía antes la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad y el artículo noventa y dos

una vez acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario

para los presos enfermos se realiza bajo estrictos criterios médicos en base

sobre los cuales instituciones penitenciarias y el propio juez de vigilancia penitenciaria adoptan sus decisiones

disfrutamos de un sistema plenamente garantista donde las decisiones no se adoptan por criterios discrecionales o arbitrarios sino bajo parámetros exclusivamente ajustados a derecho por tanto si instituciones penitenciarias no ha concedido la progresión de grado

a los presos a los que se ha hecho alusión es simplemente porque no cumple con los requisitos exigidos como decíamos en esta resolución no estamos hablando de presos vascos no intenten engañarnos estamos hablando de los presos de eta

de eta juegan los presos todos sabemos que eta se sabe derrotada y que por tanto desterrada la consecución de cualquier aspiración territorial por matar o por dejar de matar

en sus presos es decir una vez desterrada su aspiración de canjear paz por autoderminación eta ha volcado sus esfuerzos en intercambiar por presos y eta ha aceptado este último canje porque necesita una salida honrosa

ante la derrota política infringida por el estado de derecho eta no ha conseguido ninguna de sus aspiraciones ni reivindicaciones políticas y por lo tanto necesita de forma imperiosa

pero la democracia no está ni para resolver las necesidades ni las urgencias

los presos siempre han formado parte de una estrategia política perfectamente diseñada y planificada por la propia banda eta pretende presentar a los reclusos como sus propias víctimas tratando de ello de establecer una simetría en materia de sufrimientos y de responsabilidades

tratando de victimizarlos ante un estado que los mantiene encarcelados de forma injusta pero esta estrategia como decía no es una novedad es muy común en cualquier tipo de organización terrorista en definitiva los presos

frente a un estado inmisericorde ante tanto sufrimiento acumulado es decir el mundo al revés

rigen el derecho penitenciario el principio unitario sobre cualquier otra circunstancia nuestro sistema penitenciario da muestras de generosidad también con aquellos que han cometido

nuestra democracia antepone la integridad y la dignidad de las personas a cualquier otro tipo de variable y todos recordamos casos muy concretos casos

en lo relacionado con los presos enfermos ha aplicado de forma estricta los parámetros legales

no vamos a aceptar lecciones éticas en materia de derechos humanos por parte de nadie y mucho menos por parte de quien ha fecha de hoy todavía siguen sin condenar a eta señores de bildu se lo hemos dicho en muchas ocasiones la dispersión y la política penitenciaria no depende del gobierno no depende de la democracia depende exclusivamente de eta y de los presos

y entrega las armas no mediante puestas en escena circenses sino verificables por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado la dispersión no tendrá sentido

si los presos quieren que se aplique la política penitenciaria tienen que acogerse a la ley y cumplir y en este apartado el orden de los factores sí altera el producto no miren hacia fuera miren hacia dentro no exijan responsabilidades exteriores y purguen culpas basta ya de eludir responsabilidades de buscar el empate infinito de evitar condenas y simetrías inexistentes que no pretenden sino blanquear el pasado de eta

dieciseis casos individuales presentados no es mezquino utilizar la enfermedad grave o haber superado los setenta años para conseguir

tal vez para conseguir una reacción de una organización

que ustedes dicen se debe disolver en base a precisamente la presión que se pone sobre estas personas lo cual me hace a mí ver que se les puede calificar como rehenes y rehenes además en calidad política de hecho han hecho una declaración y han mostrado una voluntad y una responsabilidad pero nada parece que es suficiente

bastantes oportunidades hay una legalidad excepcional son ustedes a la que mencionan y hay otra que es la

que también es legal que también es legal y que es precisamente la que se

se dice que es una decisión en cierta manera que se aplica en parámetros ajustados a derecho

que había cumplido cuatro años de setenta y cinco por los delitos por los crímenes que todos conocemos y por estas razones fue

es esto justicia se habla de gozar de impunidad dice el señor maneiro y el señor ares dice que no colaboraremos en la desmemoria en el caso de rodríguez galindo acaso no va de la mano la impunidad y la desmemoria

justificar una violencia que es todavía presente tal vez la más dramática que se mantiene hoy en día y es la que se gestiona desde esta

penitenciaria y precisamente una política penitenciaria que la ciudadanía la enmarca como uno de los problemas principales he mencionado antes las estadísticas

entre la ciudadanía en la comunidad autónoma vasca es más negativa hoy en un cuarenta y cinco por ciento que en el año mil novecientos noventa y seis que era del treinta y seis por ciento

a lo que se está refiriendo o sea que de ceremonia de la confusión creo que la ciudadanía vasca absolutamente nada

gracias presidenta efectivamente señor arzuaga

vencedores y vencidos queremos que los vencidos sean

la ideología terrorista la banda terrorista y los que la han apoyado queremos que esos sean los vencidos y queremos que venza la democracia

la legalidad vigente la convivencia la pluralidad todo eso es lo que queremos que se consiga por lo tanto sí vencedores y vencidos debe haber justicia justicia es lo que pedimos y aplicación

para que no haya ningún tipo de impunidad usted dice que es mezquino no apoyar su iniciativa lo mezquino es seguir justificando los crímenes cometidos por eta eso si qué es mezquino lo mezquino

eso sí que es mezquino ustedes nos acusan de violencia precisamente a los demócratas que hemos padecido el terrorismo de eta violencia y el terrorismo

el de la banda terrorista y el de las personas que han venido justificando esos crímenes usted tiene la desvergüenza otra vez de hablar de humanidad de dignidad de derechos humanos de tratamiento humanitario se lo digo otra vez señor arzuaga

es decir ustedes los que han venido defendiendo cada uno de los asesinatos cometidos por eta los defensores en la nuca vienen aquí a hablarnos otra vez de derechos humanos y de tratamiento humanitario y usted viene aquí ha plantearnos qué es lo que la ciudadanía vasca quiere la ciudadanía vasca quiere justicia quiere convivencia quiere pluralidad

quiere que los terroristas pidan perdón que cumplan sus penas que colaboren con la justicia esto es lo que quiere la ciudadanía vasca quiere paz convivencia justicia verdad justo lo opuesto a lo que ustedes representan ya digo su iniciativa a favor otra vez de la impunidad

enmienda y nuestro posicionamiento político a favor de la dignidad de la sociedad vasca hau da gure zuzenketak esaten duena

vidas rotas historia de los hombres y niños víctimas de eta que ustedes han justificado más de ochocientos cincuenta asesinatos más de ochocientos cincuenta personas asesinadas por eta abuelos abuelas hijos

y niños asesinados que ustedes no han condenado a día de hoy ustedes nos traen aquí dieciséis casos individuales que ni siquiera

una inmensa mentira otra vez plagada de cinismo político absolutamente insoportable yo traigo aquí este libro que es el resumen

eta en euskadi más de ochocientos cincuenta asesinatos que ustedes no han condenado que siguen sin condenar y que siguen justificando

el resumen y no está todo si quiera de lo que ha cometido eta contra la ciudadanía vasca más de ochocientos cincuenta asesinatos historia de los hombres mujeres y niños víctimas de eta

la cara de vergüenza porque esto es lo que ustedes han justificado cada uno de los asesinatos cometidos esto es lo que nosotros vamos a defender la dignidad de la sociedad a las víctimas del terrorismo la convivencia la pluralidad el respeto a la ley la memoria la dignidad y la verdad de los hechos ocurridos frente a sus mentiras

si el estado de derecho y la democracia le ha ganado a eta

ni sus compañeros van a conseguir que se rescriba la historia que es lo que intenta

y comprendemos que para ustedes sea muy difícil pedirle a los presos condenados por terrorismo que cumplan todos los requisitos previstos en nuestra legislación penitenciaria y que reconozcan

cómo no va a ser difícil para ustedes hacerlo si ni siquiera ustedes lo quieren hacer dicen ustedes

el injusto daño causado cuestionaría el pasado político de ustedes pues cuanto antes renuncien

cuanto antes sean coherentes con lo que se han comprometido cuando se legalizaron presentando los estatutos de sortu muchas cosas también

gracias señora presidenta señor arzuaga dicen que no

que les digamos lo de la ceremonia de la confusión es que es así es que ustedes hacen un discurso

nada tiene que ver con la realidad usted ha puesto un ejemplo una persona

que es abuelo que es parlamentario pero no está en la cárcel

está en la cárcel porque fue acusado y condenado por un delito

y como esos muchos más y usted considera

por eso ustedes no condenan el pasado terrorista de eta porque lo consideran una humillación reconocer que matar a personas extorsionar secuestrar

estuvo mal reconocer eso ustedes lo consideran una humillación arrepentirse de eso es una humillación por eso

a día de hoy siguen sin condenarlo y dicen que los demás nos parapetamos ustedes son los que se parapetan siempre

y obligados porque ustedes durante mucho tiempo vendieron una idea vendieron que los que hoy están en la cárcel

para conseguir la liberación del pueblo vasco y ahora los presos están en la cárcel y han sido condenados por asesinar

que esa liberación del pueblo vasco no se ha conseguido y ustedes ahora tienen que explicar que hay de lo suyo que hay de lo suyo y por eso día sí y día también

porque no es que nosotros repitamos los debates no los traen ustedes porque ustedes de ustedes es el problema de los presos de ustedes no de la sociedad vasca

y quiere que eta deje de matar y que eta entregue las armas y que eta deje de condicionar la vida de los vascos de una vez y para siempre eso es lo que quiere la sociedad vasca

que les exigen que les vendieron que estaban por la liberación del pueblo vasco y están por asesinar por matar y por extorsionar y tienen que cumplir sus penas y tienen que cumplir la ley y se lo he dicho

este debate aquí la ley penitenciaria española es una ley avanzada es una ley humanitaria y se lo he dicho casos

de aplicación de la ley de aplicación de estricta legalidad pero aplicación de la ley que no hay recovecos

la ley y hay que aplicar la ley y si los presos todos los de eta también

tienen que cumplirle esos requisitos y ustedes siguen en lo mismo siguen en lo mismo de siempre

que no lo sé si es que no lo quieren reconocer porque es una humillación reconocerlo según ustedes han dicho pero desde luego no nos pueden dar lección de derechos humanos a ninguno

en el mejor de los casos estaba callado y en el peor estaba jaleando

no vamos a poner en cuestión las garantías que ofrece nuestra democracia existen por mucho que ustedes un día sí y un día también

y no vamos como le decía a aceptar lecciones éticas por parte de nadie en materia de derechos humanos pero mucho mejor por quienes como le decía siguen sin condenar a eta

bateratu batera bilduz señorías nada de lo que se haga desde acciones actuaciones parciales vale realmente para mejorar la calidad o la mejora de los resultados de los sistemas educativos

global en dos mil nueve pusimos en marcha las evaluaciones diagnósticas

en el dos mil nueve el equipo que yo tuve el honor de dirigir las desarrolló en el sistema nuestro reto al asumir la competencia en la consejería de educación consistió en hacer una gestión de la información de dichas evaluaciones que por una parte generara confianza suficientes en los centros sin clasificarlos y en las familias y por otra que se transformara en un motor de mejora de los resultados de los centros de nuestra comunidad es por ello que a lo largo de la legislatura anterior se puso

un plan global de mejora de los resultados escolares para el periodo dos mil diez dos mil trece dos mil catorce que marcaba

y trasladaba a los centros y a la sociedad en general la necesidad que teníamos de tener un sistema educativo no solo equitativo sino que avanzara de manera significativa hacia la excelencia de esa manera podríamos retornar a la sociedad

este plan por primera vez proponía en la educación vasca un objetivo estratégico de mejora

en una mejora de cinco puntos en los niveles de rendimiento de las competencias básicas así como un conjunto de catorce objetivos que hemos perdido de vista no los tenemos de momento encima de la mesa específicos

de que las actuaciones de la administración educativa fueran coherentes y ayudaran a los centros a su consecución dentro de este plan de mejora encontraba su encaje uno de los objetivos que marcó el isei ivei que era

en aspectos claves del sistema educativo con el fin de mejorarlo es por ello que una de las líneas de trabajo fue la de estrechar la relación con la universidad para generar esas líneas de investigación que permitieran un análisis importante y profundo de la cantidad ingente de datos que veníamos consiguiendo

qué pretendíamos encontrar cuál era la piedra preciosa que pretendíamos encontrar lo que pretendíamos encontrar era qué razones existían qué medidas se adoptaban en aquellos casos en aquellos centros educativos en lo que independientemente del isec es decir del índice socioeconómico del alumnado que entraba

que no eran proporcionales ni generales a otros centros con el mismo índice socioeconómico

que con isec más bajo con índices socioeconómicos más bajos incluso llegaban a resultados más altos que algunos centros del sistema que recogían sociedad económicamente más potente por eso hicimos la investigación entre isei ivei y departamento de educación e investigación naturalmente para ver por qué se producía eso

y la iniciamos y por lo tanto tenemos ahí un trabajo que tiene que estar realizado ya para esta fecha

lograr queremos identificar efectivamente aquellas medidas que permiten avanzar de una manera exponencial a unos centros educativos y queremos reconocer a esos centros

el resto de los centros educativos del sistema conozcan las medidas las características las peculiaridades y cuáles son los indicadores para hacer que el sistema

para hacer ese trabajo fue suficientemente consistente fue fruto de la observación científica de los resultados de las evaluaciones diagnósticas y por lo tanto tenemos que tener unos resultados fiables concluyo ya

a esta cámara de manera muy profunda y ese acuerdo es el de solicitar al departamento de educación que se mueva que nos presente el resultado de esa investigación que extienda los resultados de la misma al resto de los centros lo antes posible para que el sistema educativo vasco

de equidad pueda moverse hacia la excelencia mejorando la calidad y el resultado de sus centros y de esa manera devolver a la sociedad vasca en términos de mejora en conocimiento lo que la sociedad vasca
le aporta en recursos económicos nada más y muchas gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señorías efectivamente nosotros desde el primer momento

compartíamos la propuesta de los socialistas en relación

de ver de qué manera se puede a partir de aquí de los estudios que se han venido realizando extender esas buenas prácticas

del sistema educativo efectivamente como ha dicho la señora celaá este es un proceso que viene de atrás de la legislatura anterior un proceso

investigación que se puso en marcha que contaba con varias fases en su desarrollo y que efectivamente estamos en condiciones ya de esperar y de conocer

sus conclusiones yo hoy quería puesto que estamos de acuerdo

en el fondo y en la forma de la propuesta todos sí que quería fijarme en algunos de los aspectos fundamentales que se recogían especialmente en las conclusiones de aquella primera fase de este proyecto de investigación

de investigación donde se trataba de caracterizar esas buenas prácticas en los centros escolares lo que se llamaba de alto valor añadido las buenas prácticas que señalaban ese alto valor añadido en los centros y se trataba de centros con un alto nivel de eficacia esos centros con un alto nivel de eficacia utilizaban metodologías y recursos muy diversos y eso se señalaba

recursos diversos metodologías diversas pero había puntos

y yo esos son los que quiero señalar hoy aquí y tratar de poner en valor no respondían a un mismo canon de actuación pero llevaban a cabo actividades innovadoras en el aprendizaje de las lenguas yo creo que eso es importante

en los que se hacía una apuesta clara por la tercera lengua que dedicaban una especial atención a trabajar de manera muy importante la competencia en matemáticas y las competencias científicas

metodologías específicas de centro o de grupo de centros centros asociados en los que se han desarrollado proyectos de innovación educativa que a la vista está que dan resultados y que incluyen la elaboración de materiales propios también y que son centros además en los que queda constatado

como recurso didáctico o también como instrumento de relación interna y externa

los profesores y también por qué no señalarlo aunque en este caso efectivamente se hace referencia sobre todo a centros concertados pero creo que también hay que ponerlo en valor destacaban en esas conclusiones de la primera fase de la investigación que son centros que dan importancia al trabajo en valores de manera transversal y creo que también hay que poner en valor que además tienen la capacidad de hacerlo atendiendo a la diversidad

una gestión eficaz gestionando de una manera eficaz los recursos de que disponen pero preocupándose también sobre todo

con mayores dificultades de los alumnos de su centro que tienen mayores dificultades esto que significa pues que han dado mucha importancia al refuerzo educativo para aquellos alumnos que más lo necesitan suelen ser centros que se empeñan en la atención

del alumno y que tiene una relación muy estrecha con las familias y hay otro factor que a mí me gustaría destacar que son centros

la evaluación tiene una importancia significativa y se da una importancia enorme a evaluar a fijar y señalar resultados en las competencias y en los conocimientos de los alumnos y que no se tiene miedo a explicitar

a los alumnos y también además son centros que han demostrado que no tienen ningún miedo a la evaluación externa o a las evaluaciones que se han llamado de diagnóstico

y creo que son aspectos muy importantes a señalar a la hora de poner en valor esta propuesta hoy y por último

en los que se ha dado mucha importancia al liderazgo de los equipos directivos a su estabilidad a su continuidad en el tiempo

que eso también señala un rumbo y que fija además yo creo que de manera muy importante lo que va a ser a partir de ese momento la motivación

de los docentes en su relación con los alumnos a la hora de poner en marcha esas buenas prácticas

y ahora como decía la señora celaá se trata de que conozcamos de una manera definitiva las conclusiones una vez concluidas

las tres fases de este proyecto conocer las conclusiones

y establecer la mejor manera de aplicarlas porque no se trata de que las conozcamos yo creo que la importancia de esta propuesta es que conozcamos las conclusiones

extensivas al conjunto del sistema educativo cuáles son los planes de mejora que van a poder ser

pero necesitamos saber cuáles son las medidas previstas por el gobierno

para saber exactamente cómo tratamos de mejorar la excelencia algo que en los últimos debates

yo creo que lo hemos puesto todos en valor todos los grupos han coincidido en que nuestro sistema educativo necesita poner en valor a aquellos centros que mejor lo están haciendo

que tenemos necesariamente que buscar el ejemplo de aquellos centros que mejor funcionan y lo que es más importante como decía también la enmienda que hemos firmado todos

que más se han esforzado reconocer su trabajo por parte de la administración dedicar los medios oportunos para que ese trabajo tenga además continuidad en el tiempo y que además de manera positiva y de manera efectiva pueda ser un trabajo y un ejemplo útil al conjunto

caracterización y buenas prácticas de los centros escolares de alto valor añadido izenekoa hau da euskal herriko

que creo que es el mismo que tenemos entonces solamente una corrección efectivamente usted aquí ha venido a decir cuáles son las conclusiones que aparecen en este documento

se la ha llevado a su terreno que es el tema de las lenguas y usted dice

usted me dirá dónde pone eso lo que pone es en el tema de las lenguas es que el sesenta y siete por ciento de los centros analizados lleva a cabo actividades innovadoras en las lenguas sí

pero no pone eso en las conclusiones que nosotros o nuestro grupo tiene al menos por lo tanto el tema de las lenguas es un tema

básico importante y que aparece como primer lugar

pero no desde el planteamiento que hace usted sino desde el planteamiento de lo que nosotros defendemos y nosotros defendemos como bien usted sabe

de educación política lingüística y cultura nosotros defendemos un programa

donde el euskera sea prioritario en la escuela pero bueno de eso hablaremos cuando conozcamos las conclusiones

sí muchas gracias desde mi sitio señora presidenta por ser breve

creo que han comprendido y hemos comprendido conjuntamente la importancia que tiene lo que estamos debatiendo hoy a pesar

del runrún hemos debatido

el valor añadido es decir lo que aporta la educación acada persona no queremos un sistema educativo que sea reproductor de desigualdados no queremos un sistema educativo que sea

que sea determinista que sepa lo que los umbrales de entrada y que en consecuencia defina

queremos un sistema educativo que aporte y eso significa que el índice socioeconómico que sabemos que importa mucho

y que es indicador de buenos resultados que siga siendo indicador de buenos resultados pero que no se convierta en un predictor determinante de tal manera que la escuela que acoge

personas con alto índice socioeconómico sepa ya de manera predeterminada qué resultado va a obtener hemos visto que hay medidas

y que están importando todo el tiempo la estabilidad de los equipos directivos es una cuestión muy importante por eso trabajamos mucho ahí y sé que el departamento actual está trabajando también ahí

y muchas veces me temo que desmiga en demasía algunos indicadores sin tener en cuenta el objetivo global

a todos los grupos no se quede en una mera reflexión teórica que esta aportación sirva para la práctica

exactamente los resultados de esa investigación y que además lleguemos a tiempo para aplicarlos para el curso que viene dos mil catorce dos mil quince

antes de verano en el conocimiento y en su aplicación queremos además que el departamento de educación asuma esto con una perspectiva global

esta es una mala práctica es ineficiente porque los profesionales han de conocer lo que el sistema educativo les está diciendo y las familias también está demostrado

que cuando las familias y los profesionales intervienen en la educación los resultados mejoran exponencialmente para todo eso hemos hecho esta proposición no de ley
cuyo resultado agradezco a toda la cámara nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

dauka hitza gracias señora presidenta señorías presento esta proposición no de ley en nombre del grupo popular vasco referente a la integración en una sola
entidad de kontsumobide instituto vasco de consumo y elika fundación para la seguridad

la constitución española de mil novecientos setenta y ocho en su artículo cincuenta y uno encomienda a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces

la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos además de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios y fomentar sus organizaciones y oírlas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca el artículo diez punto veintiocho del estatuto de autonomía del país vasco

a la comunidad autónoma vasca mediante orden del veintinueve de marzo de dos mil uno se inscribe en el registro de fundaciones del país vasco la fundación instituto vasco de garantía alimentaria el fin de esta fundación de la fundación elika es informar asesorar y promover en materia de producción elaboración y consumo de productos alimentarios garantizados kontsumobide instituto vasco de consumo antigua dirección de consumo es más joven

y sus fines son definir planificar impulsar y ejecutar las políticas del gobierno vasco en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarios como pueden apreciar señorías

dirigidos a los mismos a los consumidores ambos organismos comparten objetivos en cuanto a la protección de la salud y la seguridad

y aunque cada uno de ellos tiene áreas de actuación específicas son complementarias señorías si ambos organismos

desde las puramente administrativas hasta las de investigación y si además rentabilizamos mejor el uso de los recursos públicos tenemos

y plenamente capacitado para poder involucrar a todos los agentes implicados en la garantía de la seguridad de los consumidores en su sentido más amplio a los consumidores a los que vivimos en el país vasco y muy importante a los que nos visitan o piensan en visitarnos

y condición y en muchas ocasiones nos entran y nos entra inseguridad cada vez más la situación de crisis nos hace a los consumidores más vulnerables aumenta la oferta de productos

en canales alternativos de compra este es el gran reto de la administración garantizar seguridad al consumidor

la protección de la salud la salud es el bien más preciado y donde el consumidor prioriza sus exigencias nos podemos fijar qué se hace en otras instituciones por ejemplo en la unión europea la estructura administrativa que vela por los intereses de los consumidores y usuarios tanto en la seguridad alimentaria como en el del consumo forma parte de una misma dirección general

materias qué ha hecho el gobierno de españa ha refundido el instituto nacional de consumo y la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición

organismo autónomo denominado agencia española de consumo seguridad alimentaria y nutrición no lo digo porque sea el gobierno

lo digo porque tiene lógica y sentido común porque permite abordar la protección de los consumidores y usuarios desde un único organismo

constitucional garantizando la unidad de criterio que dificulte las disfunciones y gane en eficacia y eficiencia

favorece la simplificación y sostenibilidad de la estructura administrativa cumpliéndose de este modo uno de los principios de la ley de economía sostenible

y que mantiene su compromiso con la ley y con el voto señorías esta cámara concretamente el siete de febrero de dos mil trece aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al gobierno a presentar en este periodo de sesiones

en el dos mil trece en febrero decía esto una estrategia o plan para el redimensionamiento y la racionalización del sector público de la comunidad autónoma del país vasco con el objetivo de reducir su estructura y gasto corriente así como el número total de entidades hasta su nivel óptimo con el objetivo fundamental una administración más eficiente moderna y transparente esa estrategia ha sido aprobada por el gobierno y la

no figura ni a corto ni a medio ni a largo plazo no hay voluntad del gobierno para

o redimensionar la administración pública y es por lo que desde nuestro grupo hemos presentado esta proposición no de ley por la que instamos al gobierno a que estos dos organismos se integren en una única entidad a la iniciativa del grupo popular se ha presentado se presentaron enmiendas

y el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista han llegado a una enmienda de transacción en la que francamente

se demuestra la falta de voluntad la falta de interés por reducir el entramado institucional del sector público de la comunidad autónoma vasca porque se remiten a hacer un seguimiento de la estrategia

un análisis si son ambos organismos complementarios creo que eso es obvio y por lo tanto nos parece

el segundo el parlamento vasco insta al gobierno a que optimice la coordinación entre estos dos organismos

por lo tanto pues mal hecho porque no está utilizando todos los medios por tener una coordinación optima

esta enmienda de transacción no aporta absolutamente nada es más reconoce que la coordinación entre estos dos organismos no es optima y se remite a hacer un análisis de si son complementarios y yo me pregunto grupo nacionalistas vascos ahí lo dejo pero al grupo socialista le haré una pregunta si en el gobierno del señor lópez desde la consejería de sanidad se elaboró

alimentaria qué pasa que no tenían claro que son complementarios estos dos entes no tenían

yo creo señorías que hay que tener rigor ya sé que ustedes a lo que hizo el señor lópez le pegan una patada cada día en esta cámara es que justo ha sido salir del gobierno y ha sido ir rechazando o no teniendo en cuenta nada de lo que hizo el señor lópez y el señor lópez el gobierno del señor lópez hizo cosas buenas y cosas no tan buenas pero darle una patada a todo es un poco absurdo por lo tanto señorías nosotros no vamos a votar a favor no hemos firmado esta enmienda porque no la compartimos porque no aporta nada porque no

tanto del grupo socialista como del grupo nacionalistas vascos en hacer un esfuerzo por redimensionar la administración del sector público

interés es una mera parafernalia lo que ustedes hacen aquí una mera parafernalia por lo tanto señorías nuestro grupo no va a votar tampoco a favor de esa enmienda nada más y muchas gracias

usted de hacerlo muy bien sí no se lo digo porque usted

a los que le hemos presentado enmiendas a su iniciativa siguiendo el reglamente de la cámara nos ha tachado de que estábamos haciendo una verdadera parafernalia

parafernalia por actuación pues mire usted aquí estamos en marzo del año dos mil diez la consejera

decía en esta cámara que el impulso de la seguridad alimentaria era un compromiso adquirido por el gobierno y para lograrlo el gobierno vasco apoyaría

y se valoraba positivamente el trabajo realizado por la fundación elika y sus esfuerzos de coordinación de todas las actuaciones en materia de seguridad

su iniciativa señora lópez de ocariz no la consideramos como esas iniciativas de mayor eficacia en el documento aprobado en julio de dos mil trece denominado estrategia para el redimensionamiento y racionalización del sector público de la comunidad autónoma de euskadi se establece que elika fundación vasca para la seguridad agroalimentaria es una fundación que pertenece al sector público creada en el año dos mil uno

informar asesorar y promover la seguridad alimentaria en la comunidad autónoma del país vasco la dotación fundacional fue aportada por neiker por la fundación azti por la fundación hazi

y en las observaciones y propuestas de actuación se plantea como reflexión que la misión de esta fundación es contribuir activamente a la mejora de la seguridad alimentaria de euskadi con el referente último de mantener niveles de salud óptimos en la población respecto a los criterios esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se establecen en ese plan de acción inmediata

un nuevo análisis y en lo que respecta a kontsumobide

que realiza una labor clave en la intermediación entre productores y consumidores como órgano con capacidad de arbitrio

consumidoras y usuarias y a criterio del gobierno tampoco se ve afectado este organismo por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el plan de acción del documento de estrategia de racionalización de la administración pública de ahí que se proponga mantener tal cual este organismo sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis

va en la misma línea que la traslación de la actuación que el gobierno del señor rajoy del gobierno del partido popular en el estado ha realizado en febrero de este mismo año
de forma que a través de un real decreto isiltasuna mesedez
decreto diecinueve barra dos mil cuatro ha refundido dos organismos

en un nuevo organismo autónomo denominado agencia española de consumo seguridad alimentaria y nutrición el gobierno del partido popular

en cuanto a la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios y aunque cada uno de ellos tenía áreas de actuación específicas los dos trabajaban en el ámbito de los alimentos y los dos disponían de líneas de trabajo de carácter administrativo analítico e investigación que se podían complementar

para el caso del país vasco además el pp cree que el resultado de esta fusión en el estado

y mejorará la protección de los consumidores y además este organismo reforzará la presencia de españa

en febrero de este año el consejo de ministros ha aprobado un proyecto de ley racionalización del sector público

que aligeraran su peso y para simplificar trámites administrativos y además de estos dos organismos que suprime

y también el consejo de la juventud a este proyecto de ley

pidiendo su devolución al gobierno porque dicho proyecto de ley no persigue racionalizar el sector público sino podarlo lo que va a afectar por tanto a la prestación de los servicios públicos y especialmente a los que tienen que ver con las políticas sociales y los socialistas creemos que se trata de un proyecto

porque no busca la racionalización del sector público sino eliminar o reorganizar algunas estructuras administrativas simplemente con la excusa

y esta es la excusa de intentar plantear políticas de retroceso y deterioro de todos los servicios públicos y por eso señora lópez de ocariz los socialistas rechazamos el énfasis que pone la reforma en la desaparición de órganos encargados de políticas sociales o igualdad

pensamos tal y como expresó nuestra portavoz en el congreso de los diputados

el gobierno del partido popular lo que hace es abdicar de sus responsabilidades con los consumidores españoles en momentos además de especial dificultad

un claro retroceso en españa y ustedes pretenden lo mismo en euskadi la integración del instituto de consumo hasta ahora dependiente del ministerio de sanidad en la agencia de seguridad alimentaria es una medida señora lópez de ocariz que no sirve para reducir el gasto

en términos de protección social en el acuerdo suscrito entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco

más moderna solidaria sostenible y competitiva contemplábamos la reforma de la administración para hacerla más eficaz

que el gobierno elaborará un informe en el que analice contraste y complete las reflexiones presentadas al respecto en la noveno legislatura la del señor

de cara a simplificar el entramado institucional y en aras a una mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y ese informe

en la ponencia que se ha constituido al efecto la próxima semana incluye el documento llamado estrategia de redimensionamiento y racionalización del sector público de la comunidad autónoma del país vasco y es verdad que en dicho informe no se plantea la necesidad de una intervención ni en la fundación elika

sí que parece importante tal y como señala la enmienda transada esa que usted considera un absurdo y que no aporta nada

se efectúe un análisis expreso de la complementariedad de ambos organismos además de optimizar su coordinación en todos aquellos asuntos que sean de interés común

y la enmienda esa enmienda absurda que no aporta nada según usted señora lópez de ocariz

de cada entidad que compone el sistema en base a unos modelos más eficientes de gestión

contemplábamos en el informe sobre duplicidades e ineficiencias y planteábamos

unida o al menos enlazada al tema de salud no al tema de consumo señora lópez de ocariz que creo que ahí disgrega un poco

como le decía uníamos seguridad alimentaria con salud no con consumo con salud por lo tanto señora lópez de ocariz ni patadas

ocasión de defender en todos aquellos temas que hemos tratado y lamentar que tenga que hacer usted aquí

de defender lo que el gobierno del señor rajoy ha hecho en españa y trae usted una iniciativa pensando que en fin todo vale pues todo no vale póngale usted la excusa que quiera pero todo no vale y en esta ocasión señora lópez de ocariz no estamos de acuerdo por eso

que esperemos que sea para la mejora de la seguridad alimentaria de todos los consumidores y consumidoras de euskadi muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea